la realidad de las personas sin hogar es muy diversa y desde el ámbito de las políticas sociales resulta difícil de cuantificar y de caracterizar a pesar de la imagen que se ofrece desde la sociedad no son un grupo compacto ni presentan características estables a lo largo del tiempo se trata probablemente

en un momento dado de su vida por diversas circunstancias se ven en esa situación en el último recuento nocturno de personas que pernoctan en las calles

y localidades de euskadi y que usted misma hizo público hace unos meses se señalaba que en dos mil dieciséis se habían localizado doscientos setenta y cuatro personas

a pesar de ser un dato preocupante estamos ante un descenso destacable en dicho recuento también se indicaba que el veintiocho por ciento de las personas en esa situación pasa la mayor parte del día solas y que el treinta por ciento tiene menos de treinta años

ante una problemática abordada a través de la colaboración interinstitucional ya que influyen además de la vivienda y los servicios sociales diferentes factores como el de la salud

sufren trastornos enfermedades mentales o adicciones y no reciben tratamiento médico alguno la colaboración municipal también es fundamental ya que pone a disposición centros a los que acuden voluntariamente

imprescindible resulta también la labor de los grupos de voluntarios que les acompañan las condiciones que sufren las personas sin hogar son el ejemplo más claro de la

se enfrentan a la inseguridad y en ocasiones a insultos amenazas

verbal y física por parte de otras personas esta victimización es especialmente pronunciada además entre las mujeres que tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de agresión sexual aunque euskadi dispone de un potente sistema público de garantía de ingresos

a todas las personas es preciso ahondar en este problema y buscar soluciones concretas duela gutxi hedabideen bitartez

declara haber sufrido algún tipo de agresión desde un simple comentario hasta otro tipo de situaciones ante todo este gobierno condena rotundamente cualquier tipo de agresión física o verbal a este colectivo que se encuentra en especial situación de vulnerabilidad

los datos de dos mil dieciséis demuestran que casi tres de cada diez personas sin hogar habría sufrido insultos o amenazas por parte de otras personas el robo de dinero o pertenencias constituye el segundo delito más habitual contra las personas sin hogar seguido de los timos

adicionalmente los datos correspondientes al año dos mil dieciséis muestran que un dos coma nueve por ciento de las personas sin hogar habría sufrido algún tipo de agresión sexual

dentro de unos días todas las instituciones de euskadi suscribiremos un pacto un documento de adhesión a la estrategia vasca para personas sin hogar impulsada por el departamento de empleo y políticas sociales y que ya fue aprobado por el consejo de gobiernoy la mesa de diálogo civil este hecho supondrá un positivo paso en la prevención atención y erradicación de este tipo de situaciones en una sociedad vasca que alcance las mayores cotas de solidaridad y de bienestar para ello

de la comunidad en la prevención de estas situaciones de exclusión residencial hemos establecido seis iniciativas para hacer frente a esta lacra

municipales y autonómicos para la puesta en marcha de medidas de prevención de situaciones de victimización de personas sin hogar así como la investigación y resolución de los casos que se produzcan

dirigidas a la ciudadanía en general y también a los profesionales de los servicios sociales sanitarios de justicia y de seguridad además como tercera medida desarrollaremos un sistema de alerta rápida y recogida de datos en relación a los delitos y los crímenes de odio cometidos contra personas en situación de exclusión

de formación con profesionales de los medios de comunicación para contribuir a la eliminación

en quinto lugar también vamos a fomentar la auto organización comunitaria y las redes de organización vecinal

y por último queremos desarrollar y estamos desarrollando guías y protocolos o manuales de buenas prácticas

de centros y programas de atención a las personas sin hogar etxegabetasuna murrizteko estrategia da

ahaleginaz ari gara beraz en euskadi una de cada cuatro personas beneficiarias de la renta de garantía de ingresos es pensionista y recibe un complemento de ingresos destinamos cuarenta y seis millónes de euros a este objetivo

demandamos la competencia de la gestión del régimen económico de la seguridad social contemplada en el estatuto y su gestión desde la cercanía redundará en unas pensiones

reiteramos la decisión adoptada por este parlamento instando al gobierno español a que garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible basado en el derecho a unas pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia sostenido por fuentes de financiación ciertas eskerrik asko

ere bai pero estaría bien que salga a la calle y les explique a los pensionistas

parlamentu honetara etortzea porque me da la impresión de que a ustedes por encima de todo lo que les interesa es ponerse las medallas

menos y menos si son unas propuestas progresistas y realistas guk orain arte bezala jarraituko dugu

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora iriarte dos confusiones una la primera

etorkizuneko pentsioak bermatzeko neurriak ere proposatuz bai vamos a mantener sí la prioridad social y garantizar

del sistema vasco de protección social segunda confusión no confundan ustedes a los pensionistas con lo que es el ámbito competencial de las pensiones en la comunidad autónoma del país vasco

vamos a garantizar la renta de garantía de ingresos también para personas jubiladas cuyos ingresos no alcancen el mínimo establecido en la normativa actual

el gobierno vasco actúa con rigor y garantiza seguir complementando las pensiones más bajas conforme a lo regulado en la ley dieciocho barra dos mil ocho y sí el gobierno vasco comparte el objetivo de la carta social europea que tanto se menciona pero insta al gobierno español a que garantice un sistema público

ese es el compromiso también de instar del gobierno vasco eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

históricas lehendakari jauna se da por aludido
qué iniciativas va a tomar para responder a las masivas demandas de la ciudadanía vasca eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor martínez el gobierno vasco está tomando iniciativas de forma permanente para responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía y le cito solo iniciativas de esta misma semana y que tienen relación con las cuestiones que usted plantea

red bai sarea para promover la igualdad en la empresa mesa de la brecha salarial reforma de la renta de garantía de ingresos mejora de las condiciones de las y los trabajadores públicos mesa de diálogo civil ampliación de los permisos de parentalidad a todas las familias ejemplo de lo que esta misma semana estamos haciendo eskerrik asko

señor lehendakari hoy la ciudadanía vasca ha descubierto dos cosas una ya la sabíamos

muy aficionado a sacarse fotos aparentando que pisan la calle tienen además el vicio de colgarse medallas por no hacer nada lo más triste además es que son ustedes

de verdad cree que los mismos pensionistas que han exigido a su partido que no vuelva a pactar unos presupuestos con rajoy le pondrían alguna medalla

exigían más recursos para luchar contra las violencias machistas pondrían alguna medalla al lehendakari que se saca fotos sin mujeres

de verdad cree que el profesorado el alumnado el personal contratado en educación

a este gobierno cuando están saliendo decenas de veces a la huelga contra sus políticas

de productos tubulares que están hoy aquí que están hoy en las puertas del parlamento

van a felicitarle por el abandono de su gobierno a estas empresas hay que tener valor para venir hoy aquí a colgarse medallas

que esta es la respuesta que espera la ciudadanía vasca del lehendakari cree que

aparentes el ocho de marzo y el otro día en bilbao con las pensiones esta esto arreglado

cuando la ciudadanía vasca sale a la calle las pensiones también son agenda vasca las huelgas en educación se dirigen a ustedes

a su gobierno que tome medidas ya mismo para ustedes es muy fácil decir como por ejemplo han dicho antes que estas manifestaciones son contra el gobierno de rajoy o que no tienen competencia en estos asuntos

pasar de puntillas por el apoyo de su partido a los presupuestos generales del estado mejor obviar que esos presupuestos que eran tan buenos para los intereses de su partido dejaban en la estacada a los pensionistas vascos

a su gobierno los trabajadores y trabajadoras de productos tubulares o de la naval por qué salen a la calle a exigirles que se impliquen en buscar soluciones a estas empresas esto no va con ustedes cree que la ciudadanía vasca va a comprarle esa moto de que las manifestaciones multitudinarias de esta semana

y a su partido sinceramente llevan ustedes demasiado tiempo gobernando llevan demasiado tiempo en ajuria enea y se les ha olvidado

lo que sienten la inmensa mayoría de este país llevan demasiado tiempo gobernando repitiendo una y otra vez

llevan tanto tiempo ahí que se han quedado sin ideas para resolver los problemas que

el gobierno vasco va a seguir cumpliendo la palabra dada con cercanía con realismo y con transparencia

de una sociedad vasca activa y exigente y conozco bien esas movilizaciones como las que se han producido en otras ciudades y comunidades del estado señor martínez

en euskadi vamos a seguir sumando iniciativas para fortalecer la igualdad la protección social y la atención a las personas que más lo necesitan

en el pleno de ayer de la carta social europea se garantizan mil ochenta euros al mes para todas y todos los pensionistas señor martínez

qué comunidad o ayuntamiento donde gobiernan ustedes garantizan los mil ochenta euros para los pensionistas señor martínez

creo en la evolución en positivo sumar compromisos día a día crecer décima a décima generar empleo a empleo atraer más visitantes aumentar las exportaciones lograr nuevas inversiones y trabajando juntos con realismo y con rigor no es cuestión de medallas la demagogia lo aguanta todo ustedes ustedes

cuatro años con responsabilidades públicas e institucionales gobierna o cogobiernan municipios y comunidades en los que también ha habido movilizaciones qué iniciativas han adoptado que puedan presentar aquí como modelo mire

dedicamos tres de cada cuatro euros a gastos social estos cinco años hemos incrementado los recursos de salud educación y protección social en cada presupuesto somos el cinco por ciento del estado y el cuarenta por ciento del total del gasto social

hacemos aquí lo que podemos dice que hay que hacer y no acaba de poner en marcha póngame

renta de garantía para pensionistas más prestación complementaria de vivienda más compensación por copago más ayudas de emergencia social estamos satisfechos no pero este país lidera un compromiso social que ustedes donde gobiernan solo han comenzado a transitar hitza betetzen jarraituko dugu

uno de los principales objetivos de su departamento era impulsar las políticas de alquiler

durante todo este tiempo hemos podido tener conocimiento que han reforzado programas han mejorado la comunicación para que la ciudadanía conozca la valía de esos programas

entendemos que ha sido una política diversa amplia plural pero sobre todo una política efectiva que atiende a los compromisos que este gobierno adquirió con la ciudadanía vasca hace

y medio entendemos que uno de los pilares fundamentales de la política de su departamento radica también en la ley de vivienda que está pendiente de desarrollo nos consta que están trabajando en ello y que estamos pendientes también a la espera de la resolución del tribunal constitucional al respecto de los artículos de dicha ley

para que pueda existir un pleno desarrollo de políticas de alquiler de vivienda pero me consta que no están de brazos cruzados

de que habían suscrito un convenio con el ayuntamiento de lasarte oria a través del cual dicho ayuntamiento les transfería la gestión de dieciséis viviendas municipales como todo el mundo sabe

ayuntamientos que son propietarias de viviendas que las gestionan en otros casos incluso son viviendas que en la actualidad no tienen ningún tipo de uso por tanto sí nos gustaría saber cuáles son los objetivos los principales objetivos del nuevo programa

gracias señora presidenta señor andueza como usted bien sabe y ha citado una de las prioridades fundamentales

intentar tener las máximas alternativas de viviendas suficientes para atender una demanda creciente de la vivienda en alquiler protegido es lo que nos manda la ley

del departamento y tenemos tres alternativas para poder

que estamos haciendo que estamos intensificando desde el año pasado este año y tenemos desde luego la opción de

también tenemos la alternativa la intermediación de la vivienda vacía

y tenemos también la alternativa de la prestación económica de vivienda que es un poco

de una vivienda en alquiler pues ayudar a las personas a que puedan pagar una vivienda en el mercado libre lo cierto es que la demanda que tenemos es muy alta tenemos en estos momentos

y las capacidades de respuesta siempre son limitadas nuestro parque en alquiler

asciende a doce mil quinientos veintitrés pisos que gestiona alokabide y tenemos que crecer necesariamente

se deriva fundamentalmente de que podamos ampliar la movilización de vivienda vacía

lo queremos hacer es uno de los objetivos que tenemos establecidos en el departamento hemos incrementado

estamos haciendo campañas para captación de viviendas permanentemente para intentar conseguir que la ciudadanía confié en este programa que ofrece

y de reparación de los desperfectos de la vivienda en caso de que las hubiera a finalización del contrato pero además lo que queremos es

de forma piloto hace pocos días es lo que hemos venido a decir

con el bizigune municipal este apéndice invisible nos vamos a dirigir a ayuntamientos que tengan vivienda vacía para que puedan poner a disposición de nuestra sociedad alokabide para que las gestione para el alquiler social las dieciséis primeras ya están

para que en la medida de que tengan posibilidad de poner a disposición de alokabide esas viviendas lo puedan hacer el esfuerzo a una vivienda es un esfuerzo compartido no solamente es un esfuerzo del gobierno vasco

y los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía estoy convencido de que van a abrir van a tener esta puerta abierta para colaborar con lealtad

posibilidades máximas que tengamos derivadas de la utilización de las viviendas además

toda la gestión con los inquilinos toda la relación todo el mantenimiento todo lo que supone la gestión de las viviendas lo haría alokabide hay muchos ayuntamientos pequeños y medianos que no tienen personal suficiente para destinar a la gestión de su patrimonio

y garantizamos también como al resto de propietarios del programa bizigune que van a cobrar una renta

estoy seguro de que seremos capaces de incrementar nuestra cartera de vivienda

de los municipios de euskadi muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako

egokitasunari buruz alonso jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta muy buenos días señor lehendakari señores consejeros señorías

el documento que ha remitido su gobierno a la comisión europea

usted entre otras cosas aboga por que en europa se pudiera o plantea

que es claramente contraria a los tratados a los principios fundacionales de la unión en fin al espíritu mismo de la construcción europea según la cual el ejercicio de secesión pretendido ejercicio de un derecho de secesión de lo que usted llama regiones constitucionales debería encontrar un acomodo legal

del seno de los estados que conforman la unión pues pudieran ser

esa directiva no tiene ninguna posibilidad de existir no encaja con la voluntad de la construcción europea yo le pregunto en primer lugar por qué lo ha hecho como lo ha hecho

antes de ir a un consejo europeo se produce una reunión para ver qué opinan los grupos cuando se ha celebrado el consejo

con la unión europea usted no lo ha hecho lo ha aprobado sin encomendarse a nadie sin un previo debate sin conocer nuestra opinión y lo hace en nombre de euskadi porque usted es el lehendakari y lo hace en nombre del gobierno lo ha hecho dividiendo también a su gobierno que es un gobierno trasversal y por tanto sin acuerdo con sus

yo entiendo que la única conclusión que se puede extraer de ese documento en su visión política es que no existiendo esa directiva seguir un camino soberanista es

que el grupo al que usted pertenece ha planteado en la ponencia de autogobierno en el país vasco pues sería tener la cobertura de esa directiva de claridad que usted invoca que no existe

es que mientras no exista esa directiva de claridad van a renunciar ustedes a ningún tipo de aventura ni a propiciar ningún tipo de camino soberanista ni a seguir adelante con lo que han planteado en la ponencia de autogobierno a mí eso me satisface

con esta visión que tiene usted de europa tan contraria a lo que europa es y cuáles son los siguientes pasos que va a dar

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso este documento es

con el libro blanco sobre el futuro de europa y le aclararé que también los presidentes del consejo de europa y del comité de las regiones nos invitaron al gobierno vasco a reflexionar y a aportar ideas para que la unión recupere la adhesión de la ciudadanía el próximo paso que es lo que usted me pregunta es

y a nuestros socios en distintas iniciativas comunitarias particularmente las regiones con competencias legislativas

sobre subsidiaridad y proporcionalidad que preside el vicepresidente primero de la comisión el señor

quien debe presentar un informe el día quince de julio para implicar mejor a las autoridades locales y regionales en las políticas

y el documento más allá del reduccionismo al que usted llega es completo y se presenta en seis capítulos europa social competitiva

usted solo se ha interesado por una parte de estas una parte de la sexta parte es cierto que nuestra visión política es una unión europea de corte federal que reconozca su propia diversidad y pluralidad más cercana más abierta a la participación construida de abajo arriba integrando a las regiones pueblos y naciones que conforman la realidad de europa

integrando más su mando no expulsando a nadie

una europa más descentralizada tal y como plantea el tratado de lisboa estas ideas forman parte de la visión de euskadi y del futuro de europa un documento que le
analizar en su integridad es público y está a su disposición en irekia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

tengo el documento lo hemos leído atentamente lo interesante es esa página la que yo le he citado

pero lo de la directiva es lo interesante en todo lo demás ya es un ejercicio de la

es en lo de la directiva de claridad yo le reprocho que usted no haya querido que esto se debata aquí antes de fijar la posición de su gobierno

de la visión desde la pluralidad vasca y da una imagen errónea de lo que es euskadi

eso es lo que es es oportunidades para enfrentar problemas como los que traen hoy aquí a trabajadores preocupados por su futuro

esto se podrá enfocar y se podrá hacer fíjese bien porque esta directiva está escrita en catalán

ayer y que si alguno anda con socios raros

de bildu lo que le podría ocurrir fíjese lo que le pasó a turull

por la estabilidad por construir y no por dividir eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso no se preocupe usted

mire ha destacado usted en su intervención la petición de que la unión europea no expulse a las regiones que accedan a la independencia el documento

que a usted le parece lo único importante todo lo que ha hecho referencia a los trabajadores que aquí están presentes y lo que entronca con lo que es la europa económica solidaria etcétera

y lo hacemos de manera constructiva y positiva proponemos que se habilite un procedimiento simplificado que garantice la permanencia en la unión

llevado a cabo de acuerdo a los cauces previstos en una directiva de claridad siempre y cuando el nuevo estado manifestara su voluntad de pertenecer a la unión europea planteamos una propuesta para la inclusión

democracia claridad legalidad y pacto dónde está el problema europar batasuna federal eta demokratikoa proposatzen dugu eta hainbat ekimenekin

lehendakari consejeros consejeras señoras y señores parlamentarios buenos días

dirige a europa pero vamos hablar de un documento que la sociedad vasca

al gobierno vasco el pasado catorce de marzo en la comisión de asuntos europeos y acción exterior comparecieron representantes de la coordinadora

la verdad que muy crítico con la política de internacionalización empresarial

política que ha sido presentada también por su gobierno en este parlamento es

había este tipo de cuestiones

sigue un enfoque de competitividad y rentabilidad ajena al enfoque de coherencia con las políticas de desarrollo

referencia de políticas para el desarrollo en el país vasco la política de internacionalización del gobierno vasco no llega al mínimo cumplimiento en ninguno de los dieciocho

con las que cuenta el plan de internacionalización empresarial ninguno de los dieciocho el plan no toma en consideración el enfoque de desarrollo humano
sostenible señor lehendakari qué nos tiene que decir ante este análisis muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

informados sino que diversos miembros del gobierno han sido entrevistados para elaborar este documento y también se nos presentó antes de su publicación allá por noviembre del año dos mil diecisiete y tengo que decirle que es un documento cuya contribución es interesante para el debate

del documento de internacionalización empresarial hay algunos elementos además con los cuales estamos plenamente de acuerdo muchos puntos de confluencia y

en el consejo vasco de cooperación para el desarrollo luego no solo lo conocemos sino que lo hemos debatido y lo hemos analizado además en ese documento se pone en valor el marco de referencia de coherencia de políticas para el desarrollo de euskadi se pone en valor expresamente

y es cierto que se plantean muchas discrepancias y expresiones como las que usted cita pero también hay que señalar que el análisis se refiere a las políticas de internacionalización empresarial del periodo

y por tanto en estos momentos ha sido modificada con el nuevo plan atendiendo alguno de los aspectos que aparecen en ese documento y que

gracias presidenta lamento que me haya contestado la señora tapia no porque no me vaya a contestar lo que el gobierno piensa

que tienen que ver con la materia es decir plan de internacionalización es acción exterior del gobierno vasco

que nos la presentó a nosotros en la comisión de acción exterior no sus señorías

y cooperación al desarrollo asunto del señor jonan fernández las dos

y señor fernández competencia del consejero urkullu

del lehendakari urkullu no departamento de lehendakaritza es decir o sea entonces yo hago las preguntas desde luego

las tiene que contestar y le agradezco la respuesta señora tapia porque sé que es cierto que tendrán que trabajar porque después del análisis crítico de la coordinadora del organizaciones no gubernamentales

que el palo es muy gordo ya les he he leído las cuestiones y las recomendaciones ahí están es decir reformular la política de internacionalización del gobierno vasco es que eso dicen las ong de euskadi es decir y sabemos o sea

nosotros las hemos impulsado las hemos desarrollado las hemos potenciado a través de los presupuestos también

y entonces hay una serie de recomendaciones en relación con

y eso si que me lo puede responder van a crear un centro de empresas y derecho humanos

ampliar el marco de agentes que participen en la política de internacionalización empresarial hacer más requisitos preceptivos

plantean reformular la política de internacionalización del gobierno vasco es decir hay una serie de cuestiones importantes que

el señor urkullu porque es el responsable de cooperación al desarrollo

al plan de internacionalización empresarial que es competencia directa de esta consejera que está hablando

presentó probablemente la estrategia basque country dos mil veinte en la que está la parte de las ong está la parte empresarial hacía un resumen de todo pero la estrategia de internacionalización empresarial a la cual hace referencia ese documento la que depende directamente del departamento de desarrollo económico e infraestructuras e insisto el documento hace referencia a las políticas y los programas del año

reformulada no es que la tengamos que reformular es que ya ha sido reformulada existe un nuevo plan de internacionalización empresarial y asociado a él existen nuevos programas algunos programas renovados todos considerando algunos de los aspectos que están recogidos

por tanto nuestra voluntad es efectivamente recoger esas aportaciones e introducirlas en los programas que vayamos a poner en funcionamiento en toda esa estrategia

empresarial a la que no se ha entrado a fondo a qué hacen nuestras empresas cuando están ubicadas en otros países que también es un elemento interesante a considerar es decir cómo

sino hace referencia a nuestras políticas al establecimiento de programas y ahí quiero insistir existe un nuevo plan diecisiete veinte existe un plan con nuevos programas y con algunos de los programas existentes ya renovados

egun on denoi este ocho de marzo miles y miles de mujeres en toda euskadi secundaron la convocatoria del movimiento feminista y se movilizaron en una jornada histórica manifestaron el hartazgo por la situación de desigualdad de mujeres y hombres y la violencia estructural

señor lehendakari nos gustaría saber qué está haciendo el gobierno vasco para responder a las demandas y propuestas que exigieron una vez más las mujeres vascas saliendo de forma masiva

fueron sí las auténticas protagonistas y destaco ese protagonismo en un día histórico a favor de la igualdad euskadi es pionera y referencia en igualdad

mesa de trabajo con agentes económicos y sociales para analizar y resolver la brecha salarial complementar la normativa actual para articular la respuesta autonómica frente a la violencia contra las mujeres

la propuesta de ampliación de esta prestación a todas las familias incrementar la formación y el número de personal especializado en igualdad en el gobierno vasco

las ayudas a empresas para realizar planes de igualdad la colaboración con agencias internacionales como onu mujeres para fijar los estándares para la atención de mujeres víctimas de violencia o el trabajo con agencias de publicidad y medios de comunicación para una publicidad no sexista

o por ejemplo el plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de genero eskerrik asko

eskerrik asko lehendakari le agradecemos la enumeración de todas las propuestas de su gobierno con intención de avanzar hacia la igualdad pero es que no van a la raíz pero la opinión de este grupo parlamentario le décimos que consideramos que el gobierno vasco y las instituciones no están respondiendo a la altura del momento histórico a la altura del nuevo tiempo que estamos que estamos presenciando

avanzan y desbordan las formas tradicionales han irrumpido con fuerza y no solo el ocho de marzo lo han hecho en varias ocasiones en los últimos meses han irrumpido con una nueva agenda feminista para la igualdad y la erradicación de violencias machistas una nueva agenda para estos tiempos

para este mundo globalizado una nueva agenda para este presente y con la mirada puesta en el futuro una agenda que deja sin argumentos a aquellos que opinan que ya está todo hecho y que la igualdad es un hecho y el machismo una cosa del pasado el movimiento feminista y la lucha de las mujeres ha logrado permear la agenda de los medios colocando debates conceptos y problemáticas hasta hace bien poco

ha logrado aglutinar a mujeres muy diversas plurales de todas las edades

basta ya a trabajos precarizados basta ya a las violencias machistas y basta ya a instituciones ciegas y sordas y su gobierno en cambio no se da por aludido

no cambia sus políticas de igualdad e insiste y repite lo mismo funciona con el piloto automático insiste con una fórmula que está quedando obsoleta e insuficiente una fórmula de otro tiempo la esquinita señor urkullu su gobierno no está a la altura repito

sus medidas sus políticas estaban cuestionadas en la calle

oíamos que el presupuesto del gobierno vasco para igualdad prevención y contra las violencias machistas es claramente insuficiente el cero coma once por ciento del total de presupuesto

este es el verdadero compromiso de su gobierno con las mujeres vascas el cero coma once por ciento la esquinita diga lo que quiera que no se

la lucha por la igualdad para usted señor urkullu para su gobierno no son prioritarios solo ocupa la esquinita

tuvo la oportunidad de corregir este error en los presupuestos lo debatimos el pasado octubre en este mismo parlamento a iniciativa de elkarrekin podemos pero su partido

mire usted su gobierno dice que quiere transformar el modelo educativo a través de la coeducación

con ese dinero se podrá realizar algún proyecto pero no se transforma nada pero es que luego vemos que ustedes dan doce millónes de euros a colegios del opus dei que segregan al alumnado por sexo hay que tener valor señor urkullu pero sabe por qué pasa todo esto

su gobierno no está verdaderamente comprometido con la igualdad llevan tanto tiempo gobernando que se les ha olvidado escuchar a la ciudadanía y no tienen respuestas a sus demandas

sin nadie detrás falta la ciudadanía la cercanía la foto le vale a usted pero no a los cientos de miles de mujeres vascas que queremos compromiso que queremos presupuestos dignos sencillamente llevan demasiado tiempo gobernando

legebiltzar buru andrea señora arana yo le rogaría que se deje ya de fotos

y mire la foto de su grupo parlamentario señora arana mire compartimos que estamos ante una situación de desigualdad estructural

este es un objetivo de país y contribuimos desde nuestra responsabilidad a pesar de que toda la relación de iniciativas que he mencionado antes a usted no le sirvan para nada avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres martxoaren zortziko

herri helburu bat da soy consciente del alto grado de exigencia de la ciudadanía en el objetivo de alcanzar la igualdad real y efectiva en nuestro país

las recientes movilizaciones no solo en euskadi además de llamar a nuestra conciencia nos pusieron ante el espejo del compromiso un compromiso que es

y no lo digo yo no sé en relación al compromiso de euskadi y por lo tanto del gobierno vasco de este gobierno que lleva un año

las reuniones de trabajo que mantuvo la pasada semana en new york con las organizaciones onu mujeres y el fondo de población de naciones unidas

pero si le escucha a su compañera comprobará que euskadi tiene una consideración internacional en igualdad las iniciativas aquí adoptadas son reconocidas y es conocido que euskadi se encuentra entre los primeros países europeos en el índice de igualdad

pero es justo reconocerlo señora arana y no tilde de vergüenza lo que estoy diciendo y compruébelo con su compañera y como es necesario también seguir tejiendo alianzas

el modelo de trabajo de este gobierno también en el ámbito de la igualdad berdintasunarekin kontzientziatutako herritarrak ditugula jakitun gara arana andrea

bueno en primer lugar le agradezco la explicación y también le agradezco

con los habitantes del valle de la junta vecinal porque evidentemente ese es el primer paso ahora bien

obviamente lo que ustedes buscan es una relación directa del ayuntamiento con el ministerio

no sé si eso conllevaría una pérdida de implicación por parte del gobierno no me gustaría que así fuera

ha estado en el ayuntamiento ya varias veces no han tenido respuestas satisfactorias están abandonados por parte del ayuntamiento han tenido reuniones en madrid fueron ellos mismos la junta vecinal de angiozar fue a adif en dos mil doce fue al ministerio de fomento en dos mil catorce y estuvieron incluso ellos mismos

estuvieron en dos mil quince con el departamento de transporte y también han tenido contactos con su departamento

y en ninguna de esas interlocuciones han tenido una respuesta satisfactoria en ninguna de ellas porque obviamente quién hace caso a una junta vecinal en un ministerio de un país tan grande

en madrid pues posiblemente nadie por eso yo sí creo que el gobierno vasco tiene que tener algo más de compromiso que el hecho de intermediar para que puedan relacionarse el ayuntamiento con el ministerio aquí lo que tenemos es

de trescientos vascos y vascas que hay que defender en madrid y hay que defenderla como se defendería la problemática de bilbao de vitoria

o de donostia exactamente igual son menos gente pero tienen unos problemas muy grandes y tienen unos problemas muy grandes que les vienen de la consideración

plan territorial parcial dice que es un vacío de oportunidad un vacío de oportunidad trescientos habitantes de un valle son un vacío como es un vacío y además es una oportunidad les han puesto dos vertederos dos líneas de alta tensión

una autovía y ahora un tren de alta velocidad es un vacío de oportunidad y lo hemos llenado de todo lo que no queremos en la ciudad por eso le he dicho yo que el tren de alta velocidad va de una ciudad a otra y por en medio pasa por sitios

saben que viven en el mundo rural y que van a tener menos comodidades pero no piensan que se van a llevar las incomodidades de la ciudad que es lo que les ha sucedido entonces

son como digo trescientos vascos y vascas trescientos guipuzcoanos y guipuzcoanas que merecen el apoyo del gobierno y yo sé que usted ha defendido

la suscripción de convenios para solucionar problemas urbanísticos por ejemplo los accesos a las capitales

y aquí lo que tenemos que buscar es la manera de que las peticiones vecinales sean respondidas no solo aquellas que tienen que ver con el tren de alta velocidad si están pagando todo el pasivo ambiental

tendrá que dar respuesta a esas peticiones justas fíjese

la actitud de la gente de este valle es dialogante que incluso se han ofrecido para ser angiozar

se han ofrecido a ser el lugar emblemático de la y vasca que yo personalmente

de hablar sobre esa cuestión pero es que incluso han buscado salidas de túneles especiales que han puesto en corea para reducir el ruido del tren de alta velocidad incluso les han hecho hasta parte del trabajo técnico que tendría que estar haciendo ets que tendría que estar haciendo adif lo que le quiero decir es que tienen ustedes la oportunidad única de apoyar a un valle vasco

lo único que quieren es simplemente que se solucionen problemas tan simples

de telefonía como tener una consulta médica tener una biblioteca tener un centro juvenil tener un pequeño polideportivo no están pidiendo más

esa implicación por parte del gobierno porque de alguna manera como le digo este valle está recibiendo todo aquel impacto de la sociedad vasca que nadie queremos en nuestra puerta trasera y sin embargo a ellos se lo hemos llevado

señor becerra o me he explicado muy mal en euskera o es que hoy tengo un día un poco

lo que le he venido a decir es que la forma de trabajar que hemos llevado a cabo en el tramo que era competencia nuestra que era el bergara bergara a través de vecinos ayuntamiento y ets lo queremos llevar acabo exactamente igual

no tiene capacidad de hacer esas aportaciones técnicas usted lo sabe bien

de dos formas una era hacerlo como ayuntamiento vecinos recogerlo todo y negociarlo gobierno con adif o

cuáles son las necesidades en qué condiciones las podemos plantear cómo se pueden llevar a cabo y trabajarlas pero eso no significa que porque esa mesa

y nos marchemos de la reunión nada que ver con eso todo lo contrario lo que hemos creído es

este puede ser más conveniente porque es además mucho más corto es decir no hacemos una primera reunión y luego trasladamos

ese es el objetivo que nos hemos planteado hacerlo exactamente igual que antes y que ese canal quede establecido de tal manera que

sea un camino que tenemos que recorrer a lo largo de toda la obra porque no se va a acabar con que acordemos una serie de actuaciones porque a lo largo de toda la obra va a haber más molestias porque probablemente va a haber oportunidades de hacer cosas de forma diferente como ha habido en el tramo anterior

no nos queremos ir de ahí queremos estar ahí pero sobre todo que la interlocución que en este momento ya se está detallando entre ayuntamiento y vecinos seamos capaces

usted ha planteado otras cosas que aparecen en el ptp además todo ese valle es zona rural donde tenemos oportunidad de trabajar a través del plan de desarrollo rural que también es

y que podemos trabajarlo desde ambos puntos de vista desde el punto de vista de la infraestructura

que trabajado con el ayuntamiento podemos aportar cosas adicionales por tanto es

y que nuestro compromiso es firme con continuar haciéndolo durante toda la obra y más allá eskerrik asko eskerrik asko tapia

ahora se les ha caído ayer mismo la excusa de trump porque de momento parece

pero ya veremos con qué nos salen porque realmente esto lo que demuestra es la forma de actuar y la práctica que tienen en esta empresa decía o dijo hace unos años el señor josé luís bilbao aquello de que había que tener cuidado con ordeñar demasiado la vaca que podía dejar de dar leche ojala se hubieran aplicado el cuento los gestores y los propietarios

y hay valles de demanda y en estos momentos estamos en un momento malo y efectivamente eso se refleja en las cuentas de resultados y se refleja también en la deuda que arrastra esta empresa pero si vemos el acumulado de estos últimos veinte años eso nos demuestra que esta empresa es una empresa rentable

tener visión estratégica y paciencia y a las primeras de cambio no querer depositar sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras toda la responsabilidad porque son los únicos que no tienen ninguna culpa en la situación de la empresa y si estos gestores y propietarios hasta ahora

de dividendos y no han dejado capitalización en la empresa qué decir a partir de la llegada en febrero de dos mil diecisiete del tiburón guillermo ulacia ulacia contigo llegó al desgracia

hasta la puerta del parlamento que está tratando de aplicar el abc del tiburón neoliberal no sabemos si para apretar al máximo las tuercas o para desmantelar progresivamente

es que es cíclico que tiene momentos mejores y momentos peores y que hay que tener visión y paciencia

que trabaja suministrando un producto muy determinado y bajo unas condiciones muy determinadas y que para que eso pueda seguir haciendo el binomio acería laminación debe seguir

prestar el producto a los demandantes a los compradores un producto de calidad un producto bajo demanda un producto en tiempos adecuados y con las debidas homologaciones y para eso es necesario el mantenimiento del empleo y de la actual estructura productiva

ni un despido en pt eskerrik asko casanova jauna

luego el impacto sobre la situación del conjunto de tubos reunidos puede ser menor de la que esperábamos la pasada semana es momento

de establecer un plan de viabilidad y de tomar acciones y me consta además que los trabajadores

han hecho un esfuerzo muy grande por implantar medidas de eficiencia de mayor productividad y de mejora de la situación y además lo han conseguido a lo largo de este año qué no ha sido suficiente es posible pero

total y absoluta siempre de acompañamiento sin olvidarnos que la responsabilidad mayor está donde está propiedad

eskerrik asko presidente andrea señor lehendakari señorías señora consejera

elaborado y publicado hace poco un estudio elaborado por la cátedra de ciencias políticas perdón cátedra de políticas educativas de la universidad camilo josé cela el país vasco nuestra comunidad autónoma

en la clasificación de eficiencia y eficacia educativa

de conocerlo dice que hay una decena de comunidades autónomas que invierten en educación

pero este estudio denuncia diferencias considerables también entre las diecisiete comunidades autónomas analizadas en eficacia eficiencia y equidad educativa dicho de otra manera lo que viene a decir que el dinero invertido no rinde tanto a los que más

varias clasificaciones en función de esta eficiencia analizada por un lado en un extremo distingue a regiones comunidades autónomas que gastan poco y que lo hacen regular

a pesar de un modesto nivel de inversión a estos dos grupos los califica como grupos de alta eficiencia existe un tercer grupo que obtiene bajos resultados a un coste superior

y lo que apunta según el trabajo esto leo literalmente a problemas de calidad de la gobernanza del sistema educativo este es obviamente el grupo que peor parado sale en la clasificación y lo conforman murcia extremadura y el país vasco este es el origen

le hago señora consejera lo que viene a concluir el estudio es que este resultado en esta baja eficiencia que nos equipara

el nivel de calidad de las políticas y su grado de eficiencia

el hecho de que se obtengan bajos resultados e insisto sigo leyendo prácticamente literalmente

claramente a problemas de calidad de la gobernanza del sistema educativo en términos comparativos entre comunidades autónomas

cabe concluir que el país vasco debería centrarse en políticas educativas de carácter general destinadas a elevar el nivel de rendimiento de todos los alumnos y en este sentido

entre otros la pregunta clara señora consejera se da usted por aludida eskerrik asko sémper jauna jaurlaritza uriarte andrea zurea da hitza

de una manera directa con espacios comunes con desiderátums y con reflexiones más o menos globales pero estamos hablando de algo que es extraordinariamente grave y que además esta

del sistema educativo vasco que de un tiempo a esta parte numerosos indicadores apuntan que algo no funciona correctamente que hace falta

y cuando la consejera del ramo a la que están anunciando continuamente que tiene que cambiar que tiene que hacer algo que tiene que tener algún tipo de impulso político y que tiene que buscar complicidades en esta cámara también por qué no además de en agentes sociales que por cierto se le manifiestan una vez

algo sucede y entonces no valen ya los subterfugios plantee en esta cámara soluciones
comparta con los grupos las soluciones eskerrik asko sémper jauna uriarte anderea zurea da hitza

la educación en valores desde una visión integral de la educación es decir apostamos por una escuela inclusiva equitativa e innovadora de calidad que avance hacia la excelencia somos conscientes y lo hemos dicho de los resultados de las últimas de evaluaciones para lo cual estamos tomando medidas iniciativa global de formación implementación de modelo educativo pedagógico los planes de mejora las bases para el acuerdo de educación

en un diagnóstico de nuestro sistema intentemos por favor no dar una información sesgada la apuesta en la inversión de un sistema no se miden únicamente por el resultado de unas competencias

la apuesta de nuestra educación se ve también en otros resultados e indicadores

estamos entre las tres comunidades autónomas con menor tasa de repetición tenemos el porcentaje más alto de población entre treinta y treinta y cuatro años que ha completado estudios terciarios tenemos el porcentaje más alto de escolarización de dos años casi duplicando la media del estado

además de formar a nuestros hijos e hijas también es objetivo la empleabilidad en su futuro

en el ámbito de inserción laboral de los jóvenes en dos mil diecisiete el ochenta y cuatro por ciento de los jóvenes que han finalizado la formación dual de formación profesional han sido contratados al día siguiente

muy por encima de la media estatal y de la unión europea setenta y cuatro coma tres

por ciento españa nuestra inversión en educación no olvidemos además la inversión en transporte escolar en comedores becas cero tres años

también da estos resultados tenemos a nuestros jóvenes en el sistema escolar se forman obtienen sus títulos se colocan

debemos seguir trabajando y eso sí lo hemos dicho una y otra vez para mejorar nuestros datos hacia la excelencia

tenemos claro que nuestros datos avalan que apostamos por no dejar a nadie en el camino repito una educación para todos y para todas la educación es demasiado importante como para ser objeto de intereses partidistas

egun on como ya sabe usted porque además llevamos hablando dos días en este parlamento de esta cuestión en las últimas semanas y últimos meses estamos viviendo un proceso de movilizaciones importantes contundentes y generalizadas en el conjunto del estado y de manera particular aquí en euskadi

es decir que garantice unos ingresos suficientes para mantener una vida digna a nuestras y nuestros mayores a quienes acceden por su edad a la jubilación y a quienes tienen derecho a las pensiones públicas

unas pensiones capaces de garantizarles una vida digna es decir adecuadas y adecuadamente actualizadas esto en realidad

y a los gobiernos que cumplan la ley piden por lo tanto una cosa tan sencilla como que los gobiernos y la administración pública cumplan con sus obligaciones

estas protestas han sido activadas y promovidas por las víctimas directas de la degradación

intencionada del sistema público de pensiones las y los pensionistas y jubilados son conscientes de la dura situación que sufren en sus carnes y han tomado la iniciativa han comenzado a movilizarse están organizados y están convencidos de la necesidad de pelear por sus reivindicaciones hasta el final la lucha que han decidido comenzar nuestros mayores

sino que es una lucha por un sistema de pensiones público digno no solo para ellos sino también para el resto de generaciones que por imperativo biológico llegaremos tarde o temprano a la edad de jubilación es por lo tanto una lucha solidaria la que están realizando nuestros mayores una lucha

y todos y que por lo tanto tiene que ser en nuestra opinión respaldada y apoyada

no solo por las organizaciones políticas sindicales sociales etcétera sino también por las instituciones y por los gobiernos por todos los gobiernos

públicas dignas que está en marcha es consciente de que está defendiendo los derechos de todas y por la consecución de ese sistema público digno para el presente y para el futuro también es cierto que el detonante que ha hecho prender la mecha de la movilización

ha sido concretamente la pérdida del poder adquisitivo de los actuales pensionistas y la situación precaria que se empieza a extender de manera generalizada

toda una vida trabajando para encontrarse ahora sin poder llegar a fin de mes

en euskadi como en otros lugares este ha sido el detonante que ha hecho que lo que empezó con concentraciones en diferentes localidades por parte de quienes ya no aguantan más entre nuestros mayores se haya convertido en un potente movimiento que desborda las calles y ocupa portadas en los medios de comunicación

porque esta pérdida de poder adquisitivo que sufren debido a las perversas reformas aprobadas en el sistema público de pensiones caen sobre una situación ya precaria con anterioridad más de la mitad de los pensionistas en euskadi están por debajo de los mil euros

y de estos la mayoría cobran menos de seiscientos cincuenta euros

del mundo es una situación de precariedad absoluta aunque ya sabemos que a usted en particular le parece que seiscientos cincuenta euros para vivir no está tan mal

de aquella afirmación en euskadi hay más de medio millón de pensionistas de los cuales por lo tanto

de ese salario mínimo interprofesional los complementos que algunos de ellos cobran a esas pensiones raquíticas en nuestra comunidad vía renta de garantía de ingresos

de todos estos el mensaje de que tenemos que defender la reforma necesarias para conquistar un sistema público de pensiones que nos garantice una vida digna hasta el final de nuestros días

con el acuerdo alcanzado en esta cámara el pasado uno de marzo a iniciativa de nuestro grupo parlamentario pero nosotros aún no tenemos claro si ese mensaje

forma parte es cierto que esta mañana el lehendakari nos ha dicho que el gobierno vasco asume ese mensaje y asume

su responsabilidad si ese compromiso del gobierno vasco va a ser firme

y ya de paso aprovecho la ocasión para preguntarle qué opina su gobierno del que usted forma parte de otras medidas que se quedaron en el camino por no ser aceptadas por el principal socio del gobierno el partido nacionalista vasco

de las bases máximas de cotización y la eliminación de las desgravaciones fiscales a la contratación de planes privados de pensiones

ayudarían a la mejora de ese sistema público de pensiones y al aumento del grado de solidaridad en el mismo

nosotros pensamos que debería haber un compromiso serio por parte de los

dicho acuerdo para no traicionarlo bajo ningún concepto y eso pasa necesariamente entre otras cosas porque quienes votamos aquella iniciativa de marzo

como la actualización de las pensiones por debajo del incremento del ipc del coste de la vida mi coalición desde luego va a cumplir ese compromiso y espero que los demás grupos que llegaron a ese acuerdo también lo cumplan pero también nos gustaría saber qué opinión tiene su gobierno sobre una posible aprobación de los presupuestos generales del estado

y que afectan a las y los pensionistas entre ellas como le digo la subida de las pensiones de tal manera que las mismas continúen perdiendo poder adquisitivo

habrán llegado a la conclusión de la importancia entre otras cosas de plantar cara a los presupuestos que lo vayan a posibilitar en la práctica nuevamente nuestro grupo

si han analizado ustedes en profundidad las duras consecuencias que están teniendo en las condiciones de vida de las y los pensionistas esa subida

y si lo han analizado no sabemos a qué conclusiones han llegado y si entre ellas está esa importancia a la que me he referido

nosotros sí nos gustaría conocer estas cuestiones de la mano de la responsable de las políticas sociales en euskadi señora artolazabal que no solo los partidos y coaliciones aquí y sobre todo en el congreso tenemos un papel a este respecto pensamos que también nuestro gobierno aquí en euskadi debe tener una actitud proactiva para respaldar las medias necesarias para revertir las negativas consecuencias del ataque que está sufriendo el sistema público de pensiones de intereses privados y por eso queremos saber señora artolazabal qué posición y qué acciones concretas va a desarrollar el gobierno del que forma parte usted para respaldar y ayudar

que ya ha explicitado este parlamento como necesarias el pasado uno de marzo puedan finalmente ponerse en marcha eskerrik asko

gracias al esfuerzo social para consolidarlos como pilar fundamental

el gobierno vasco no tiene competencias en materia de pensiones ese debate se ha de dar en el marco adecuado partiendo de los principios de suficiencia y sostenibilidad

los planteamientos deben ser honestos y buscando el mayor consenso para garantizar la estabilidad de las medidas y acuerdos además defendemos la actualización de las pensiones en base al ipc demandamos la transferencia a euskadi de la competencia del régimen económico de la seguridad social

se gestionan mejor desde administraciones más cercanas a los problemas de la ciudadanía y euskadi constituye un ejemplo de ello conscientes de la situación de las personas con pensiones más bajas complementamos sus ingresos a través de la renta de garantía de ingresos

el lehendakari hoy mismo lo decía y ha recordado la petición de la transferencia de la gestión del régimen económico

dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad y todo ello mediante un convenio tal y como establece la disposición transitoria quinta del estatuto de gernika en estos momentos de las cincuenta y nueve mil doscientos seis unidades convivenciales que son beneficiarias de la renta de garantía de ingresos quince mil doscientos setenta y nueve son pensionistas es decir un veinticinco coma ocho por ciento

mensualmente se abonan cuatro millónes de euros a las unidades convivenciales pensionistas debemos ser conscientes y consecuentes con lo que los datos aportados implican las prestaciones de nuestro sistema de garantía de ingresos son las que más directamente se centran en la población en mayor situación de riesgo un noventa y seis coma seis por ciento del gasto de renta de garantía de pcv y de aes llega a este colectivo ustedes también gobiernan en otros lugares

y qué medidas van a adoptar en los mismos para corregir o para solucionarlo son precisamente esos límites del sistema general de protección del estado los que han dado sentido al sistema de garantía de ingresos de euskadi nuestro sistema aporta un cuarenta y uno coma siete por ciento de los ingresos de la población que se enfrenta a situaciones de pobreza real una aportación que es casi el doble del veintitrés coma dos por ciento que corresponde al conjunto de los ingresos

bien sea pensiones desempleo u otros creo que disponemos de suficientes datos en euskadi como para conocer la situación de las personas pensionistas que viven aquí

precisamente nuestra sociedad percibe en euskadi las pensiones más altas del estado

no es la primera vez que venimos a hablar de dignificar las pensiones y lo haremos cuantas veces haga falta con tal de avanzar en el debate necesario para conseguir consensos para conseguir

adecuada pero son necesarias ya

y este no es el marco es otro marco en el que se tiene que llegar a analizar a evaluar y a debatir

poder adquisitivo y sigan contribuyendo al avance y economía del país asimismo hay que plantear medidas para que se garanticen las pensiones de mañana es necesario actualizar el sistema a fin de consolidarlo y hacerlo viable para generaciones futuras porque así lo exigen la inversión de la pirámide demográfica

y la situación de los salarios y tenemos que superar la reforma laboral para posibilitar mejores empleos con mayores aportaciones a la seguridad social a nuestro entender

tal y como se concibe y sin ningún otro condicionante la ley aboca a una bajada drástica de las percepciones que se haría aun más evidente a partir del año que viene con la entrada en vigor del factor de sostenibilidad en esta cuestión también nos alineamos con la proposición no de ley debatida el uno de marzo pasado

en el año mil novecientos ochenta y nueve debemos alcanzar un amplio consenso en la edificación de este sistema fundamental para la cohesión social y justicia social

a que garantice un sistema público de pensiones suficiente y sostenible en un derecho a las pensiones dignas en un marco de solidaridad y transparencia y sostenido por fuentes de financiación ciertas es algo en lo que estamos de acuerdo y en lo que estamos

entiendo por lo tanto que o de sus palabras deduzco que el compromiso del gobierno del que usted forma parte con las medidas que

es firme si lo entiendo de sus palabras así lo entiendo incluso de lo que ha expresado el lehendakari esta mañana por lo tanto y ese era el motivo de

si usted ha escuchado que yo sé que ha escuchado mi intervención anterior es preguntarle precisamente qué acciones qué posición va a tener el gobierno respecto a una cuestión muy concreta una de las medidas acordadas en este parlamento a la que usted ha hecho referencia y ha dicho que están de acuerdo y que su compromiso es firme con la misma

es la de no subir las pensiones por debajo

como pasa actualmente algo que pasa o que para que tenga que pasar nuevamente tiene que ser aprobado en los presupuestos generales del estado y esa es la parte concreta sobre la que yo quiero interpelarle al gobierno hoy

qué acciones va a hacer el gobierno vasco de cara a los presupuestos generales del estado en relación con esto más allá de decir que está de acuerdo con la cuestión

también lo dije ayer en esta cámara pensamos que

todos los actores tenemos que tener una actitud activa en la defensa de esas medidas y cuando digo todos los actores no me refiero solo a los grupos políticos y no me refiero solo a los grupos políticos en el congreso de los diputados me refiero en concreto y por eso esta interpelación al gobierno

que nuevamente tengamos unos presupuestos generales del estado del partido popular que entre bastantes cuestiones negativas en nuestra opinión para la ciudadanía

subida del cero coma veinticinco por ciento para las y los

yo espero que ese compromiso del gobierno sea firme y se materialice también en el combate a esos presupuestos negativos para la sociedad

convendremos en reconocer la actitud del gobierno si efectivamente no mercadea con esos presupuestos y no traiciona esta cuestión

pero para nosotros esto es importante esos presupuestos entre otras cosas van a permitir que se siga sucediendo esto y por lo tanto nosotros preguntamos si el gobierno
tiene intención de tener una actitud activa en esta cuestión nada más muchas gracias eskerrik asko hernández jauna

zurea da hitza señor hernández yo creo que confunden
las cuestiones que tienen que ver con el gobierno con las cuestiones que hoy tienen que ver con los partidos políticos y por tanto sí que nosotros como gobierno

en las diferentes instituciones para obtener las mejores ventajas para el pueblo vasco lo harán en base a las

que estimen tenemos en esta sociedad yo sinceramente creo necesario que tenemos que escapar de los debates partidistas cuando hablamos de consolidar y garantizar

que con tanto esfuerzo hemos logrado no cabe demagogia alguna en este asunto de vital importancia para nuestra sociedad y para los de nuestros pensionistas

no más de dos meses nos visitaba una compañera suya la consejera responsable de políticas sociales de la comunidad de castilla la mancha que junto con su equipo venía a conocer y recoger experiencias de lo que desde euskadi estábamos realizando en el ámbito de la protección social y

querían que les explicásemos que les mostrásemos que les detallásemos cuáles eran las estrategias que desde nosotros

sobre todo las que estaban dirigidas a los sectores más vulnerables y también los más desfavorecidos

y nos elogiaron por lo que aquí en euskadi estábamos haciendo en concreto la renta de garantía de ingresos y también

la preocupación que teníamos por los colectivos a los que iban destinadas

por tanto señor hernández no hagan demagogia diciendo en un lugar una cosa y en otro escenario distinto otra aquí estamos trabajando en serio y cuando usted ha dicho que traicionamos

que lo que hacemos es velar por los intereses de todas y todos los vascos y buscar las soluciones que mejoren la calidad de vida de los que vivimos aquí

ya lo estamos haciendo y además creo que son dos cosas diferentes una lo que tiene que ser complementar las rentas

establecer unas cuantías mínimas de las mismas no se puede pretender suplir

la de aliviar una situación puntual de vulnerabilidad de las personas para que no caigan en la pobreza y para que no se queden atrás

del régimen económico de la seguridad social y esto no es un capricho ni es una reclamación puntual esta solicitud es un llamamiento al cumplimiento de una ley

como he trasladado en mi primera intervención nos sumamos al acuerdo adoptado en la sesión celebrada el uno de marzo de dos mil dieciocho relativa a la propuesta del gobierno de gestionar aquí adecuadamente la seguridad social y las pensiones y nuestro compromiso

comparto la necesidad de garantizar un sistema público de pensiones suficiente y sostenible que esté basado en el derecho a unas pensiones dignas en el marco de la solidaridad y la transparencia que esté sostenido por fuentes de financiación ciertas que además garantice que esas pensiones sean dignas y predecibles

la ley veintitrés barra dos mil trece reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revaloración del sistema de pensiones de la seguridad social

restableciendo la vinculación al ipc como fórmula de actualización de las mismas en este país hemos sabido aunar fuerzas y llegar a consensos importantes y la reclamación de una mayor capacidad de autogobierno nos ofrecerá garantizar la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía vasca

pero mientras no se dé la transferencia el debate de cómo garantizar un sistema público de pensiones estable que favorezca la cohesión social y evite la situación de exclusión ha de darse donde corresponde mientras tanto vamos a mantener la prioridad social por lo que el gobierno seguirá actuando con rigor y garantizando el cumplimiento y el complemento de las pensiones más bajas conforme a lo regulado

no es ya que no compartamos ese planteamiento es que no se sostiene por sí mismo si no explíquenos usted para qué queremos tener más hijos e hijas los vascos

esa generación de jóvenes tan preparada de la que tanto alardeamos continuamente

o el que hay es tan precario que optan por marcharse para poder desarrollar su proyecto de vida su departamento a través del gazte plana y en la estrategia dos mil veinte plantea principalmente dos

luego es verdad otra serie de medidas complementarias pero de menor calado digamos que esas son sus medidas estrellas ustedes incentivan el acceso a un primer empleo con lehen aukera

una primera experiencia laboral en unas condiciones tales que lleva a que los y las jóvenes cuando

de quienes ya trabajan en los mismos puestos de trabajo cuando el primer sueldo de lo que ingresan los y las jóvenes vascas

cuando los jóvenes vascos necesitan al menos el cincuenta y tres por ciento de su sueldo

a una vivienda y esto nos lleva a la conclusión según varios estudios a que la juventud vasca debería cobrar el doble para poder independizarse en solitario por lo tanto mire usted el reto que tenemos por delante eta hori da gazteen enplegua sustatzeko

y en cuanto a la segunda medida estrella que su departamento puso en marcha

para incentivar dicho contrato los datos son de suspenso el contrato relevo es verdad que creció en dos mil dieciséis un nueve por ciento pero las

relevos que se firmaron en dos mil dieciséis solo treinta y uno

se acogieron a dicha subvención por lo tanto como he dicho la calificación no puede ser otra que de suspenso zentzu horretan

el setenta y uno coma cinco por ciento de los vascos menores de treinta años viven con sus padres

estamos ante una pobreza encubierta ya que más de ciento trece mil vascos la mayoría entre dieciocho y cuarenta y cuatro años no pueden independizarse por falta de ingresos suficientes eso es una pobreza encubierta y decía usted el otro día que los jóvenes optan por el alquiler yo le decía no es que opten es que no les queda otra ya que ser joven y propietario de una vivienda es una anbizio handiagoarekin

y le expliqué los objetivos que este gobierno y en relación con la juventud vasca teníamos

y hoy volvemos de nuevo con ello no ha pasado ni una semana y

la situación en la que se encuentra la juventud vasca los problemas que tiene y sus expectativas de futuro

el empleo la vivienda y la educación son los ámbitos de mayor relevancia en esta legislatura dentro de las políticas que realizamos para esta franja de edad estas mismas áreas son las que componen el primer eje del cuarto gazte plana en materia de empleo nos hemos

y el objetivo es incrementar las oportunidades laborales para las personas jóvenes facilitando la primera experiencia laboral

ya en el año dos mil diecisiete hemos conseguido que seis mil ochocientos veinte personas jóvenes se incorporen al mundo del empleo

acercar la edad de emancipación a la deseada por nuestra juventud

desarrolla en todos sus centros y etapas para todo el colectivo juvenil con el objetivo de encaminar su futuro hacia la inserción laboral

un empleo de calidad y desarrollar una carrera profesional para optar a la emancipación mediante una vivienda es precisamente la vivienda

y esos son los principales problemas a los que se enfrentaba la juventud de euskadi el año pasado y que recogíamos con detalle en nuestros documentos para seguir avanzando en el estudio presentado en el mes de julio del año pasado retos de la juventud de euskadi dos mil diecisiete los jóvenes vascos menores de treinta años establecían como una de sus principales preocupaciones el hecho de hacer frente a los problemas ligados al mercado de trabajo y los problemas económicos

pero ellos mismos son los que nos han dicho que el empleo el acceso al mercado de trabajo y los problemas económicos son los que más les importan señor estarrona y por tanto

una de nuestros retos aparte de otras es el

también figuraba como preocupaciones principales pero en un segundo lugar la vivienda la educación y la salud

y secundaban la necesidad de incentivar políticas en estos tres ámbitos específicos en el del trabajo en el del empleo en el de la salud también en el de

por todo ello hemos establecido unos objetivos estratégicos en las diferentes áreas que incentivan la puesta en marcha de un proyecto de vida independiente para la juventud de euskadi respecto al empleo en el plan se proponían cinco objetivos estratégicos como ya le comenté con dieciocho líneas de actuación y cuarenta y dos iniciativas prioritarias dentro de estos cinco objetivos que entendemos prioritarios para mejorar la situación del empleo en euskadi el primero sería

porque es preciso reducir el tiempo que transcurre desde que se finalizan los estudios y se comienza a trabajar y por ello actuamos en diferentes ámbitos como la innovación en el empleo centrándonos en la sensibilización y compromiso de los empleadores también estamos trabajando en el desarrollo integral del sistema de formación dual y en la adecuación de la formación a la demanda del mercado laboral otro de los ejes en el que estamos trabajando en que estamos trabajando es el del empleo y la calidad

estamos facilitando las primeras experiencias laborales de la juventud e impulsamos la contratación de personas jóvenes con experiencia y mejoramos las oportunidades de empleo además promovemos la capacitación orientada a la mejora de las condiciones de empleabilidad

formando oportunidades y fomentando oportunidades laborales para personas jóvenes en sectores estratégicos de la comunidad así como en la formación para la activación

que requiere información y comunicación con el fin de reducir la siniestralidad

también queremos más jóvenes emprendedores y para eso el impulso del emprendimiento supone que a más personas jóvenes

y en el ámbito de la inclusión laboral para personas jóvenes en riesgo de exclusión también estamos

el objetivo estratégico sin duda de dar oportunidades a estos jóvenes para evitar situaciones de exclusión

específico se trata de algo más de intenciones señor estarrona son cinco objetivos estratégicos para uno de los sectores primordiales para la juventud de euskadi que es el empleo

conseguir más opciones de acceso a la misma para el colectivo joven para ello se establecerá desde el departamento de vivienda una reserva preferente de vivienda protegida

medidas y orientadas a favorecer el alquiler juvenil es un

y para eso estamos focalizando las necesidades que los jóvenes tienen a la hora de emanciparse porque su propósito es tener una mayor opción a la hora de acceder a una vivienda pero para esa ansiada emancipación es precisa la correcta educación de la juventud y en euskadi

en el que estamos trabajando también valores como son la paz la convivencia la igualdad el respeto la prevención de la violencia de género

son otro de los ámbitos a trabajar dentro de la educación y consiste conseguir más jóvenes plurilingües dentro de nuestro sistema para ello

seguiremos trabajando en la igualdad de oportunidades en el sistema educativo facilitando el acceso la permanencia y la finalización de los estudios principalmente

incidimos en el modelo de la escuela inclusiva vasca por último impulsamos el papel de la juventud investigadora y para ello

y apoyaremos a las personas jóvenes investigadoras para fomentar sus carreras sobre todo también en el ámbito de la mujer joven empleo

son los tres ingredientes necesarios para lograr que la juventud de euskadi pueda desarrollar su proyecto de vida independiente y ese es el objetivo que persigue el cuarto plan joven

en colaboración con el resto de los departamentos del gobierno algunas serán nuevas y otras serán programas ya existentes y algunos

no ha obtenido los resultados para eso estamos haciendo un análisis

trabajadores que se acogen a dicho contrato tenemos una juventud formada la mejor formada de la historia de nuestro país

participé y no lo dije yo lo dijeron otros representantes son precisas nuevas oportunidades para que lo demuestren y ello es en lo que estamos trabajando

con el fin de que logren sus objetivos vitales y que ocupe su lugar dentro de nuestra sociedad pero todo esto señor estarrona se lo comenté hace una semana en la comisión

del cuarto gazte plana y desde luego de una semana a aquí yo

con el objetivo de ayudar a los jóvenes vascos a conseguir sus retos de futuro mila esker eskerrik asko artolazabal andrea

ese es el problema ese es el problema que usted aquí ha venido nos ha leído una retahíla de dieciocho medidas concretas cuarenta y cinco acciones pero

todos y todas sabemos que misma receta mismos resultados yo creo que una de las cuestiones más importantes que quería poner hoy aquí en el debate o quería sacar en el debate es

de ser conscientes y de plantear medidas y soluciones para la juventud desde el nuevo paradigma ante el que nos encontramos el consejo económico y social vasco así lo recoge también y supongo que usted lo habrá leído señora consejera y también anima a que realmente

para poner un plan de choque de manera urgente

y que algunos de los partidos aquí presentes rechazaron y eso el consejo económico y social de euskadi también lo plantea por lo tanto seguramente y creo que maddalen iriarte a la mañana lo decía seguramente ustedes vendrán dentro de poco con un plan de choque

no a petición de euskal herri bildu y luego sí que es

del plan de juventud que dice que las cuestiones relativas al empleo constituyen hoy uno de los motivos de reflexión una de las preocupaciones principales añade que el paro es percibido hoy por las personas jóvenes como una auténtica lacra social que dificulta su desarrollo personal y su plena integración social y luego habla de la nueva configuración de una nueva cultura del trabajo la necesidad de fortalecer los itinerarios de inserción laboral

y sobre vivienda dice que es uno de los aspectos nucleares en el actual diagnóstico sobre la juventud

pues bien son unos pasajes del plan joven de la comunidad autónoma vasca de mil novecientos noventa y nueve un plan joven que se diseñó hace veinte años un plan joven

de la comunidad autónoma vasca de dos mil dos dos mil cinco del tercero y de este cuarto que usted aquí nos presenta

cómo la situación y los problemas de la juventud en este país veinte años después siguen siendo lo mismo por lo tanto esto nos lleva

que realmente los planes jóvenes que se han presentado y que se han puesto en marcha las estrategias y las medidas que los diferentes gobiernos autonómicos han puesto

en marcha no han servido para nada o por lo menos no han sido capaces

y nuestros jóvenes y no me quiero alargar mucho más simplemente el consejo económico y social lo apunta y nosotros también

de ese plan de choque de ese plan de choque necesario talka plan

arazoei erantzuna emateko y que es necesario que nos pongamos todos y todas a trabajar para

artolazabal andrea zurea da hitza señor estarrona nosotros ya venimos trabajando

con las asociaciones con el resto de colectivos que algo tienen y quieren aportar en el ámbito de la juventud y por tanto

seguro que todos los planes son mejorables yo lo reconozco y además

lo manifiestan pero también quiero ser justa para también demostrar que la situación que los jóvenes vascos tenían hace diez años no es la misma que la que tiene ahora y me refiero por ejemplo al índice de desempleo que usted ha demostrado en una de esas cartulinas en el que

en este momento estamos con tasas del quince por ciento seguimos teniendo

en el que avanzar tenemos que seguir también trabajando en la calidad de ese empleo pero también me tiene que reconocer que la tasa de desempleo en euskadi en el ámbito juvenil ha bajado y ha bajado de una forma importante

yo lo que le he contado es lo que le trasladé en la comisión pasada y que las novedades ya se las trasladé en aquel momento pero sí que me gustaría igual en esta situación y teniendo la oportunidad de hablar

de plantearle una serie de resultados que sí que hemos

si somos objetivos creo que han sido unos resultados buenos

seguramente que mejorables teníamos previsto a lo largo de la legislatura ofrecer

oportunidades a jóvenes en cuatro años

en el año dos mil diecisiete el número de jóvenes que han accedido ya a

por ejemplo cuatrocientos noventa y ocho han participado en el programa lehen aukera

han accedido a un primer empleo tras la finalización de la formación dual o también

lo han hecho finalizando perdón estudios de formación dual tanto en la universidad como en la formación profesional y han participado en experiencia practicas

en el mundo educativo al mundo laboral asimismo ochocientos treinta y cuatro jóvenes menores de treinta y cinco años han sido contratados mediante los planes locales y comarcales de empleo y esto es por citar solamente algunos de los ejemplos desde las diferentes administraciones y también

estamos trabajando usted lo decía antes en la primera intervención no

medidas concretas estamos también queriendo reducir la tasa de paro juvenil y como le decía ha habido un notable descenso de la misma pero también en el ámbito de la vivienda se están adecuando las bases de acceso a la vivienda protegida con el fin de facilitar

habiendo experiencias pilotos para facilitar la emancipación mediante alquiler compartido y por tanto seguimos avanzando

realizado por el consejo económico y social de euskadi mi departamento ha participado en los foros creados durante la elaboración de ese estudio

nuestro objetivo como gobierno es claro mejorar la situación de la juventud en euskadi no solo usted se compara

lo hacemos para saber en qué situación nos encontramos e identificar buenas prácticas que logren mejorar la situación de nuestro colectivo social más joven y hay cosas en las que tenemos que avanzar

e insisto el empleo la vivienda y la educación son los tres pilares fundamentales para que logren esa emancipación lo más satisfactoria posible lo que queremos para la juventud de euskadi es que esta sea lo que quiera ser

que desee siempre sobre esas bases de valores de formación solidaridad y sostenibilidad que caracterizan a la nueva juventud de la europa avanzada mila esker

una mujer sola con cuatro hijos tres niños y una niña

sola por haber tenido que huir de la violencia machista con una orden de alejamiento sola y sin red familiar de apoyo saben lo qué ha hecho lanbide

el castigo estándar un mes sin prestación a pesar de no existir en el actual régimen sancionador

motivos haberse retrasado al comunicar un par de ingresos de la pensión alimenticia y por lo tanto no hacer valer sus derechos económicos artolazabal andrea

sobrevivientes de violencia de género todo lo contrario señora guanche

no hay que olvidar que para las víctimas de violencia de género el miedo es un freno para la denuncia así como para la dependencia emocional y económica en algunos casos también la vergüenza al qué dirán y otra serie de factores condicionantes de incertidumbre

las instituciones tenemos que estar ahí para acompañarle y protegerla estamos ahí haciendo valer sus derechos para ello se ofrecen las ayudas de pago único hacia una nueva vida

y lanbide también establece criterios más flexibles en las condiciones para el acceso a la prestación así como para el cálculo de aquellos ingresos no computables

entre ellos la pensión de alimentos de esta manera se facilita la protección a las víctimas además se conceden las prestaciones previstas en la rgi que en su caso implican

situaciones con respecto a la población general perceptora al aplicarse criterios más flexibles en las condiciones de acceso a la prestación como puede ser que solo deben acreditar

en lugar de tres o tener dieciocho en lugar de veintitrés años exigidos al resto o que se les excepciona del requisito de constituir una unidad convivencial como mínimo de un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud

que haya sido otorgada precisamente por ser víctima de violencia de género o que en casos excepcionales se acepte la no reclamación de la pensión de alimentos a su expareja si existe un informe del servicio social

cuando hablamos de reconocimiento de los derechos recogidos en la ley de garantía de ingresos ello conlleva una serie de obligaciones

lo que se está tramitando desde el departamento y desde lanbide es en cumplimiento de la normativa existente y en este caso por duro que parezca se ha aplicado la ley

la verdad señora artolazabal es que diga lo que diga esto es una absoluta vergüenza sencillamente intolerable

me sé esto es una muestra de que ustedes en el centro no ponen a las personas esto es un compromiso vacío con todas esas mujeres valientes a las que usted nombraba qué cree que sienten las mujeres que sufren violencia machista cuando le oyen decir que lo que se ha hecho es cumplir la ley

se sienten solas y sienten que nadie las va a ayudar este caso ha saltado ahora a los medios de comunicación por una resolución al ararteko resolución en la que lanbide este gobierno responde que da igual cómo se encuentre la persona que recibe la ayuda que las obligaciones se cumplen y punto que no entienden que la mujer no reclame la pensión de alimentos a su pareja agresora que incluso saben que el maltratador sí tiene ingresos y que puede pagar la pensión puesto que a él sí le pagan religiosamente su rgi

que independientemente de la loable labor que estén realizando otros servicios de otras instituciones públicas lanbide también ha realizado sus actuaciones en orden a la inclusión social de la reclamante de verdad

el problema son sus prioridades para ustedes el control un control pésimamente entendido está por encima de las personas es este el gobierno del bien común del auzolana que nombraba el lehendakari hace un rato esto es violencia desde la administración con las personas más vulnerables y sí lo ha oído bien violencia le guste o no escucharlo no lo digo yo lo dice amnistía internacional que define

a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos humanos le recuerdo que este parlamento a iniciativa de elkarrekin podemos ya exigió por unanimidad informes que revisen los procesos de

informe que ya estaba comprometido en el año dos mil quince este es el compromiso de su gobierno con las violencias machistas porque de momento y estamos a dos mil dieciocho

ze lotsa artolazabal andrea ze lotsa sabemos de sobra que entre las obligaciones de las personas está comunicar ingresos o cambios pero en serio no son capaces de mirar más allá no es de aplicación a estas mujeres la excepcionalidad recogida en el documento de criterios que habla de causas de fuerza mayor

usted me contará qué es lo que entienden ocho documentos ha presentado esta mujer pero no solo es eso cómo son capaces ustedes de no valorar la colaboración con los servicios sociales dónde están las unidades de género que tienen que atender a las mujeres víctimas de violencias machistas de forma específica dónde

atentas y vigilantes y denunciando cada abuso de lanbide

si este es el rumbo que han decidido tomar nos van a encontrar al frente tal vez demasiado tiempo en ajuria enea

porque esta actuación no es humana señora artolazabal así no así no eskerrik asko guanche andrea

isiltasuna mesedez yo desde luego señora
guanche no he venido aquí a hacer política barata para poder acusar

de lo que no es verdad a la hora de gestionar cómo tenemos que gestionar las rentas de garantía de ingresos o cualquier otra prestación de la que estamos obligados a gestionarla de una forma adecuada

y que somos los demás los tiranos que no nos preocupa nada y que no tenemos corazón a la hora de poner o de tener en cuenta las situaciones

el suyo a pesar de llamarme casi sin vergüenza

espetado si el gobierno vasco está presidido

en sus medidas y confían en el trabajo de cara a seguir beneficiando y protegiendo a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país y de los que vienen de otras comunidades y de otros países

ha incumplido los compromisos que ha adquirido esa persona como beneficiaria de la prestación no presentó comunicación alguna sobre sus ingresos

de las carreras encaminadas al ámbito científico o industrial

sobre esa materia yo lo que les dije a las cuatrocientos personas la mayoría jóvenes y sobre todo mujeres que

entre las muchas cosas que dije es que no se autoexcluyesen

con qué parte de esa frase usted no está de acuerdo eskerrik asko

y me devuelva la pregunta las mujeres

autoexcluimos de ser directoras de plantas industriales no nos autoexcluimos de ser directoras de bancos centrales tampoco es autoexclusión

el número de mujeres que dirigen grupos de investigación al treinta y tres y que en las cátedras no lleguemos al veinticinco no se llama autoexclusión no somos las mujeres las que nos autoexcluimos de los premios nobeles lo que usted

y es discriminación es la discriminación que han sufrido las mujeres científicas cuando no se reconocen sus logros y además cuando muchas veces se les atribuyen a los colegas masculinos los méritos que ellos no dudan

no se autoexcluyó cuando descubrió un cometa y sin embargo se lo atribuyó a su marido y desde luego cuando lisa meitner fue colaboradora en el descubrimiento de la fusión nuclear pero el nobel solo se le dio

que cuando rosa green franklyn hizo los avances para conocer el adn pero sin embargo

las mujeres que según sus palabras como sería mi caso no nos hemos autoexcluido también le podríamos contar mucho sobre los sesgos que ocurren en la contratación

porque usted lo que hizo aquel día fue una frivolidad lo mismo que fue una frivolidad decirlo en esos términos cuando por ejemplo las investigadoras intentaban ir a la antártica a investigar

porque no había ni tiendas ni peluquerías y como el tema es muy serio creo que lo tendríamos que tratar así y además le voy a invitar a que lo tratemos así a partir de ahora

que trata este tema o lea usted también los informes que hay del parlamento europeo

de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas y género y todos los informes le van a decir lo mismo y efectivamente que ahora en estos momentos hay una pérdida para toda europa porque las mujeres no estamos en esos ámbitos porque tenemos que tener no solo

sino que además tenemos que gozar de las mismas oportunidades de trabajo y que nuestra contribución sea igualmente valorada y eso es lo que ocurre eso es lo que ocurre no es una auto exclusión porque no es igual por ejemplo en investigación aunque ha aumentado en número de mujeres que participan en la investigación sigue siendo menor pero desde luego siguen siendo bastante mayor el porcentaje que hay en investigación pública que en la privada

de que las mujeres tenemos tendencia a escoger los empleos peor pagados parece ser que el sector privado tiene tendencia

en los empleos mejor pagados señora consejera yo creo que hubiera sido muy distinto su discurso sí usted se hubiera comprometido creo que esa es su tarea a eliminar los obstáculos culturales e institucionales

y si se hubiera comprometido también a superar los estereotipos también conscientes e inconscientes que padecemos señora consejera nos hubiera gustado que su discurso

cambios en las instituciones para acabar con la segregación vertical y para fomentar la participación de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones

no se autoexcluya y desde luego colabore para que parte de la sociedad deje de excluir a las mujeres y con mucho interés le contestaré siempre

eskerrik asko mahaiburu anderea usted lo ha dicho es una frase correspondiente a un titular de prensa

casi cuatrocientos jóvenes la mayoría de ellos mujeres yo participé en ella

claro que esta no es la propuesta que formulamos como solución a todos los problemas que tenemos yo creo que tenemos que ser serios señora larrion

está usted haciendo mención a un titular un titular ceñido a una sola frase de una intervención

una frase con la que sí que estoy de acuerdo porque esas mujeres que estaban allí y además porque me lo trasladan a la hora de hablar con la gente de la universidad cuando se

en algunas ocasiones se autoexcluyen porque entienden

aquello no va a ser algo que a ellas les pueda

se cambió la denominación de la carrera de informática se le añadió el título de ingeniería de informática y eso hizo que el descenso en la matriculación de la mujeres fuera evidente y manifiesto

que en todo momento demostraron interés y atención a lo que allí se contaba y debatía yo desde luego

no las considero ni frívolas sino simplemente fueron hechas en el contexto

en el que el auditorio ya llevaba mucho tiempo trabajando y analizando y desde luego yo no creía que mi forma de actuar de cara

potenciar iba a ser la forma más adecuada soltándoles si se me permite la expresión un discurso que nada ellas me iban a entender por tanto lo que sí que hice fue animarles para que sigan trabajando yo lo que sí que hice fue animarles para que siguieran trabajando

que aprovechen todo el abanico de posibilidades que se les presenta en un momento tan crucial como es el de decidir a qué rama área o modalidad van a encaminar su vida y que no descarten cualquier proyecto profesional al que pueden aspirar

tenemos que seguir trabajando por una sociedad que equipare y consiga mayores cuotas de igualdad
tanto en las tareas productivas como en la reproductivas debemos seguir eskerrik asko artozabal andrea denbora gehiago eman dizut

tenemos que seguir trabajando para que la tasa de desempleo

gracias señora presidenta egun on guztioi el nueve de enero

en el que se reflejaban los viajes de los hijos de los presos de la banda terrorista eta para ver a sus padres en la cárcel eso sí

por los que estaban condenados no se mencionaban en ningún momento en el programa se omitía de forma totalmente intencionada que estaban en la cárcel por asesinar por extorsionar por amenazar que estaban en la cárcel por terroristas por qué no se cuenta esto por qué no se cuenta el dolor

cuándo hemos visto un programa de etb en el que el protagonista haya sido el dolor de los niños que han perdido a sus padres o de padres y madres que han perdido a sus hijos a manos de eta

por qué ese empeño permanente de ponerse del lado de los verdugos de los terroristas cómo es posible que una televisión pública pagada con el dinero de todos los vascos emita un programa dedicado a los hijos de presos de eta para presentarlos como víctimas

y no me mande al consejo de administración pero su departamento tiene un contrato programa con e i te be en virtud del cual esta se compromete

a contar la verdad y a estar a favor de la deslegitimación del terrorismo cree que etb lo cumple eskerrik asko llanos andrea zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkideok señora llanos me voy a atener a la pregunta que me había enviado usted por escrito deduzco que

una pregunta relativa a un documental que hacía referencia a las pensiones que algunos pensionistas cobran

tengo la impresión de que la pregunta en el consejo de administración no la satisfizo y viene aquí

su único objetivo es generar igual se ha confundido no sé su único objetivo es incrementar crear un ambiente de sospecha sobre e i te be y sobre la actividad de los profesionales del ente y esta vez viene con el argumento de que

no se emplea lo suficiente en la deslegitimación del terrorismo

la observo cuando sube aquí los viernes y la verdad es que dice cosas tremendas y no consigo entender quién le ha otorgado a usted ese grado de superioridad moral

que le hace sentirse superior a la mayoría de sus conciudadanos y conciudadanas vascas y no nos haga trampa porque con esta acusación que hoy trae usted lo que está haciendo

es cuestionar el desempeño profesional de una periodista que ha puesto su imagen y su firma en las entrevistas que realizó para ese documental usted no sé pero yo desde luego no tengo ningún motivo para sospechar de la actitud

y ética de esa informadora lo tiene usted eskerrik asko zupiria jauna llanos andrea zurea da hitza

gracias de nuevo señora presidenta señor consejero le he puesto el ejemplo anterior le pongo el ejemplo al que usted hacía referencia el ejemplo de poner a un

a un huido de eta como ejemplo de los jubilados vascos como si no hubiera otro ejemplo para poner

para ponerlo de ejemplo de las precariedades que están pasando los pensionistas vascos y es lo que le digo

que etb se ha convertido en un instrumento a favor del relato y no es una cuestión de superioridad moral no no en absoluto es una cuestión de realidad de en lo que se ha convertido etb de qué es un instrumento en este momento etb

debiera de ser un instrumento a favor de la deslegitimación del terrorismo y es un instrumento de todo lo contrario de abonar un relato del empate infinito de la equidistancia infinita de querer comparar los sufrimientos como si fueran comparables y eso es injustificable señor consejero

pagada con el dinero de todos los vascos incurra una y otra vez una y otra vez en abonar

y que tiene firmado con este con su gobierno con el departamento

por eso le digo señor consejero deje de mirar para otro deje de quitarse de encima responsabilidades que le corresponden que le corresponden a usted

para que etb cumpla con sus obligaciones de deslegitimación del terrorismo deje ya de echar balones fuera y de acogerse a mi supuesta superioridad moral que no es en absoluto simplemente para no contestarme en etb hay una intención constante

constante y usted debería de decir algo su gobierno debería de decir algo no puede pasar siempre

siempre en esta cámara porque lamentablemente una y otra vez usted lo que hace

ante las preguntas de la oposición eskerrik asko llanos andrea zupiria jauna zurea da hitza

presidente andrea señora llanos no voy a pasar de largo creo que no lo hago habitualmente

que además de sorprenderme su actitud me desagradan profundamente su actitud su tono y su agresividad permanente que no comparto ni comprendo

la forma en que ha planteado usted el tema me plantea a mí y me genera una serie de preguntas que para mí son importantes

usted está planteando cuestiones que buscan la adopción de medidas de censura que en mi opinión son francamente preocupantes

tiene el ciudadano ángel alcalde derecho a dar su testimonio

al margen de su pasado tienen los periodistas y las periodistas de este país la obligación de saber quién es ángel alcalde quién es ángel alcalde para que impongamos a todos los informadores de este país la obligación de conocerlo es el señor alcalde al margen de su pasado un ciudadano que a día de hoy tiene asegurados sus derechos por la constitución

tiene alguna limitación quién lo ha decidido cuándo consideraremos rehabilitada a una persona que haya saldado las deudas que haya tenido en el pasado con la sociedad y con la justicia cuándo lo decida la justicia o cuándo lo decida usted

de condena por terrorismo por delito de robo por fraude

desde luego creo que esa última palabra no nos corresponde tenerla ni a usted

areetako biderantz zaintza lanak egitera joateko el objetivo primordial de este eje era visibilizar

que sostenemos las mujeres cotidianamente de forma remunerada o no y hacer presentes a todas las mujeres que más allá de su voluntad no pudieron hacer huelga

porque dejémoslo claro aquellas que más invisibilizadas están aquellas que tan precarizadas están aquellas a las que se les aplican las políticas discriminatorias ellas no pudieron hacer huelga en la mayoría de los casos o porque no tenían quien cuidase de esas personas a las que asisten en el hogar

en domicilios privados o porque se les aplicaron unos servicios mínimos abusivos como muy bien decían las mujeres que salieron a la calle el ocho de marzo este sistema sigue generando una división sexual en los trabajos invisibilizando

aquellos que tienen que ver tanto con profesiones feminizadas como con la sostenibilidad y el cuidado de la vida la crianza la educación

la atención de personas con dependencia las redes de apoyo mutuo

y no inclinarse hacia adelante utilizar ayudas mecánicas cuando estas existan realizar formaciones especifica de movilización de personas dependientes

colocar nuestro cuerpo lo más cerca posible de la persona a movilizar

evitar flexionar o girar el cuello quién da esta formación con esto nos sirve con estas afirmaciones nos sirven

que incluso nos hicieron reírnos por no llorar de todo lo que estaba aquí escrito utilizamos las palabras de las trabajadoras del hogar

a las trabajadoras interesadas y al mandato parlamentario

no se ha divulgado de ninguna manera y ni siquiera está colgada junto al resto de las guías en la página de osalan en todo caso no sería una guía de difusión adecuada para este sector pero no es extraño que la guía esté escondida

ni es completa ni asegura ninguna formación

tienen una segunda parte en la que se resume la legislación laboral

el gobierno vasco tenía hasta noviembre para hacer un diagnóstico de la situación de las trabajadoras de hogar en euskadi no se cumplió ha pasado más de un año desde que se acordó y seguimos sin diagnóstico encima en una resolución posterior

sobre si incluir a las trabajadoras del hogar en las ayudas de conciliación de las que ahora están excluidas ayudas en mejorar su situación ya se lo respondo yo

son el único colectivo discriminado y por lo menos quitaríamos de nuestro ordenamiento una medida discriminatoria contra este colectivo de trabajadoras pero bueno sigan con la investigación y de mientras las trabajadoras siguen excluidas hasta cuándo tendremos que esperar tres en tres diferentes ocasiones en dos mil diez en dos mil once y en dos mil catorce

en el control del empleo del hogar y de las agencias de colocación gaur egun oraindik ez da honelako kanpainarik egin ez da inolako

hay que pedir explicaciones y nosotras se las pedimos a usted

pero ahora está en su mano y tiene mucho que hacer y una infinidad de oportunidades para trabajar beraz ze neurri hartuko dituzu etxeko langileen lan baldintza eta

quiero expresar con rotundidad que para el departamento de trabajo y justicia y para mí misma la situación de las personas trabajadoras del hogar es una preocupación de primera magnitud por otra parte le digo que es un asunto complejo en el que

para lograr lo que usted propone que es dignificar las condiciones y los derechos laborales de las personas trabajadoras de hogar voy a tratar de analizar la situación teniendo en cuenta diferentes ópticas como la laboral la legal

y también pondré al día a este parlamento de las acciones que estamos llevando a cabo desde el conjunto del departamento también voy a referirme a las proposiciones que se han aprobado por esta cámara y los pasos que estamos dando para cumplir con los mandatos parlamentarios efectivamente el dos de febrero de dos mil diecisiete el pleno

a realizar un diagnóstico de la situación de las personas trabajadoras del hogar en la comunidad autónoma vasca incluyendo en el estudio tanto a las propias trabajadoras de hogar

en la misma proposición no de ley se instaba y vuelvo a citar textualmente a que desde osalan se elabore un estudio que defina con la mayor claridad posible

recopile los pasos que hasta la fecha se han venido dando por las diferentes instituciones y plantee las medidas a aplicar hemos entendido que a pesar

que los estudios se podían unir en uno solo y por eso

quien se ha responsabilizado de su elaboración sobre esta primera cuestión ya he tenido oportunidad de responderle en alguna otra iniciativa parlamentaria

la complejidad que supone concretar y definir el colectivo de personas trabajadoras de hogar dada

que lo envuelve sin embargo desde que se aprobó la referida proposición no de ley en osalan se pusieron a trabajar sin tratar de matizar lo que suponía el alcance real

de aquella iniciamos el trabajo en base a recursos humanos propios

contamos con datos casi exclusivamente de siniestralidad y somos conscientes de que estos incluso son limitados con el ánimo de elaborar un buen estudio que permitiera cumplir con el mandato parlamentario nos pusimos en contacto

de la facultad de ciencias sociales y de la comunicación de la universidad del país vasco cuando formulamos la solicitud de propuesta al departamento universitario quisimos dejar bien patente la metodología y el alcance de la misma la metodología debía ser activa inclusiva y participativa

de los grupos representativos de las personas trabajadoras del hogar el objetivo es

lo más precisamente posible la dimensión del problema recopilar datos de lo realizado por las distintas instituciones y plantear las medidas a aplicar para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras

en el plan de trabajo presentado por el departamento de sociología y trabajo social para elaborar el diagnóstico y que ha sido consensuado con osalan se contempla la realización de un trabajo de campo con entrevistas tanto a personas empleadoras como a quienes trabajan en el servicio doméstico y a empresas que ofrecen este tipo de servicios están previstas

y diez grupos de contraste dirigidos a los tres colectivos descritos en el caso de que se considere necesario está previsto incluir un proceso de encuestas específico para el proyecto además se van a analizar las diferentes fuentes documentales estadísticas del instituto nacional de estadística y del eustat y estudios relacionados que han sido elaborados por entidades como emakunde observatorio de las ocupaciones del servicio público de empleo estatal y otras publicaciones sociológicas

dará lugar por supuesto a los informes diagnóstico y medidas demandadas el acuerdo al que hemos llegado con la entidad que va a elaborar el estudio es que

en el momento en el que podamos ofrecerles avances concretos así lo haremos posteriormente el once de mayo de dos mil diecisiete ustedes aprobaron una nueva proposición no de ley en la que instaba textualmente al gobierno vasco a que dentro del estudio a realizar por osalan acordado en la proposición no de ley aprobada el dos de febrero de dos mil diecisiete valore los efectos que tendría

del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez del veintinueve de junio

de las trabajadoras de hogar a acceder a las prestaciones en caso de excedencia o de reducción

señora etxebarrieta estoy segura de que es plenamente consciente de que el primer estudio requiere la intervención fundamentalmente de sociólogos y que el solicitado en segundo lugar en la segunda resolución del parlamento necesita un estudio desde el punto de vista

con el ánimo de satisfacer la voluntad de esta cámara de adoptar medidas que garanticen los derechos de las personas trabajadoras de hogar algo con lo que estamos absolutamente de acuerdo

por lo tanto estamos hablando de dos estudios que son complementarios aunque realmente las conclusiones de uno y de otro no tienen por qué ir absolutamente ligadas por lo que cuando tengamos datos de este último lo haremos llegar al parlamento para su análisis y valoración

que una de las dificultades que tuvimos para encargar estos estudios a entidades externas

por eso le he comentado que comenzamos los trabajos con personal propio

le he dado cuenta de las dificultades con las que nos encontramos para subsanar esta circunstancia en el presupuesto de osalan para el ejercicio dos mil dieciocho se ha aprobado una partida destinada a tal fin

en su intervención como es la guía de la seguridad y salud en los trabajos del hogar puedo asegurarle que antes de que se sustanciara la comparecencia de representantes de la asociación de trabajadoras de hogar ante la comisión de trabajo y justicia se habían detectado por parte de los responsables de osalan elementos de mejora

la dirección del organismo tomó la decisión de elaborar

y en estos momentos se ha concluido su elaboración y se encuentra en fase de edición y traducción al euskera y en breve será remitida a todos y todas

siniestralidad sobre la siniestralidad en la interpelación le hacía ver

cómo el computo que hoy en día se estaba haciendo no se reflejaba con la realidad de las trabajadoras del hogar y bien sabiendo la complejidad que puede tener el conseguir este tipo de datos estaba por una parte la participación de osakidetza en la detección

de los accidentes que se daban en el ámbito doméstico y en esto también todavía tenemos mucho que hacer o todo que hacer porque no se están dando datos desde

por otra parte estaría la posibilidad de poner dentro de las estadísticas anuales se desconoce o no se tienen datos suficientes para dar datos sobre los accidentes laborales que se dan en el ámbito del trabajo doméstico porque lo que estamos dando es una imagen

accidentes laborales dentro del ámbito doméstico zuzenbidearen ikuspegitik bigarren azterlana egitea bai

que hay elementos de mejora en esta guía muchos elementos de mejora y que se plantee una nueva guía nos parece bueno por lo menos adecuado

que las trabajadoras del hogar y las personas expertas puedan participar

ese fue uno de los problemas a la hora de acabar con lo que tenemos aquí bizkaiko etxeko langileen baimenarekin

señora etxebarrieta creo haber dejado patente el interés del departamento de trabajo y justicia de cumplir con los mandatos parlamentarios y por aportar lo que esté en nuestra mano para hacer visible una situación que comparto tiene

que junto con los estudios requeridos vamos a incorporar medidas que contribuyan al objetivo que todos pretendemos

estará de acuerdo en que estamos tratando de un asunto complejo ya lo hemos repetido pero complejo desde el punto de vista legal

y desde hace tiempo debería haberse resuelto por eso

el tiempo necesario para presentar unos trabajos exhaustivos y realistas tanto usted como yo somos conscientes de que en el ámbito de la comunidad autónoma vasca

planteadas pero también sabemos que otras tienen que alcanzarse a un nivel superior me estoy refiriendo a la ratificación del convenio

o la recomendación doscientos uno de la misma institución tal y como sus señorías dejaron patente en aquella proposición no de ley del dos de febrero de dos mil diecisiete

que en breve les haremos llegar esa nueva guía de prevención de riesgos laborales en el servicio del hogar familiar sí que me gustaría

modificados o ampliados con respecto al anterior en primer lugar se ha comenzado definiendo con más claridad el concepto del servicio de hogar familiar

por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar así como otras normas de seguridad social

con el único fin de centrar con mayor precisión la cuestión aun no siendo el objeto principal de la guía que está centrada en la prevención de riesgos laborales se ha modificado e incorporado nuevas fichas como las de los riesgos

iluminación o la temperatura o con los agentes biológicos

intentando abarcar con ellas todas las posibles medidas que podrían facilitar la eliminación o atenuación de los diferentes riesgos se han incorporado dos anexos a la guía un compendio de

empleados en el desempeño de las labores del hogar y por otro unas recomendaciones relacionadas con la manipulación manual de cargas

para finalizar una mejor comprensión de los términos empleados en la guía

problemática compleja repito que necesita de la intervención de diferentes agentes institucionales y sociales dentro de nuestro propio gobierno pero también de otras instancias

escuchar al colectivo estudiar y aplicar las medidas oportunas en el departamento de trabajo y justicia no están radicadas todas las competencias que pueden hacer posible el objetivo pero no tenga duda usted ni tampoco el colectivo de personas trabajadoras del hogar de que tendrán toda nuestra colaboración

muy feminizado cuenta con una especial atención por nuestra parte comprometidos como estamos

brecha salarial precariedad laboral fraude en la contratación y otros como bien sabe estamos actuando con las herramientas que tenemos para superar
todas estas situaciones no deseadas besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

bienvenidos los trabajadores de productos tubulares que ojalá no tuvierais que estar aquí

de que estéis aquí defendiendo vuestros puestos de trabajo con esa determinación que estáis demostrando determinación que yo creo que le van a exigir a este gobierno y también en concreto

pretende llevar a cabo un proceso de restructuración triple de despido colectivo modificación sustancias de condiciones de trabajo e inaplicación de convenio colectivo con el que pretende eliminar puestos de trabajo y empeorar condiciones de trabajo

con plantas en amurrio y trápaga venían denunciando la destrucción de empleo en plantas productivas tanto de personas eventuales como de subcontratas

la política laboral del grupo ha sido denunciada sistemáticamente por los sindicatos en los últimos años algo que entendemos ustedes conocen o deberían conocer

se extiendan también a amurrio estamos hablando

e inducido en riesgo inspección de trabajo y su departamento deberían en nuestra opinión jugar un papel en defensa de los derechos de los trabajadores

ustedes el pasado mes de enero le realizamos una pregunta para su respuesta por escrito sobre el seguimiento que han realizado ustedes a esta cuestión y no nos han respondido nada hasta el punto de que la mesa ha aceptado un recurso de amparo para que ustedes

por eso hoy tenemos que insistir y preguntarle de manera genérica pero directa si ustedes como otras veces le hemos interpelado desde nuestro grupo en otros conflictos se van a poner de lado de los trabajadores y van a tener una actitud

hace usted referencia a la opción que ha tomado el grupo tubos reunidos por un proceso de restructuración laboral y ha descrito con precisión en qué puede consistir debo indicar que a día de hoy no se ha presentado organismo dependiente del departamento de trabajo y justicia comunicación alguna a este respecto por lo que a efectos administrativos no se ha producido ningún hecho que permita el inicio del ejercicio de las competencias que tiene el departamento que dirijo no obstante lo anterior somos conocedores

y de las denuncias públicas de los trabajadores por lo que compartimos nuestra preocupación por el futuro del grupo tubos reunidos y por productos tubulares la adopción de medidas de regulación de empleo por parte de las empresas

suspensión temporal del contrato o de extinción de las relaciones laborales exigen el seguimiento de un determinado procedimiento en el que interviene la autoridad laboral la autoridad laboral es la garante del cumplimiento de todos los requisitos

lo mismo que la modificación sustancial de condiciones de trabajo y la inaplicación del convenio colectivo

la legislación laboral vigente es para recordar tal y como he hecho en otras ocasiones que la reforma laboral realizada por el gobierno del partido popular eliminó y lapidó una gran parte de las competencias que hasta entonces correspondían a la autoridad laboral

como que los expedientes de regulación de empleo sean de suspensión o de extinción es necesario

rompe el equilibrio necesario que debe existir en la regulación de las relaciones laborales existe un claro desequilibrio en la negociación colectiva que afecta

a la modificación de las condiciones laborales y a muchas cosas más no interprete señor hernández que en este gobierno o que este gobierno no actuará ante lo que nos pueda presentar el grupo tubos reunidos le aseguro que no haremos dejación de las competencias que desde el departamento de trabajo y justicia tenemos en estas materias

no interpreto señora san josé precisamente les pido que hagan eso no es suficientemente con hacer un seguimiento que es lo que usted nos ha dicho hay elementos suficientes en este momento sobre la mesa para que

actúe y actúe con rotundidad suficientes elementos se están vulnerando los derechos de los trabajadores se están vulnerando bastantes derechos

la empresa ha puesto sobre la mesa que pretende hacer un proceso de restructuración y les ha dejado plantados a los trabajadores en la puerta de un hotel el día que iban a empezar a hablar eso es una vulneración del derecho de información y del derecho de negociación y por lo tanto su departamento ya puede actuar

con servicio mínimos abusivos como han denunciado los propios trabajadores

que no se encargan de elementos necesarios para la comunidad por lo tanto hay elementos suficientes para que ustedes actúen y además la ley obliga a las partes a negociar de buena fe y es más que evidente que los gestores de esta empresa no

de buena fe y por lo tanto ustedes ante eso ya pueden actuar hasta el punto que la empresa no está actuando de buena fe

que puede ser perseguida por ustedes perfectamente con arreglo a la legalidad no se puede permitir

una persona que ocupa una responsabilidad así con subalternos eso es una vulneración
de derechos laborales muy grave y que ustedes pueden actuar eskerrik asko hernández jauna san josé andrea

lo que hace siempre trabajar de manera rigurosa estudiando profundamente cada una de las cuestiones que se nos planteen y poniendo a disposición de las partes

al acuerdo entre la dirección y los representantes de los trabajadores y que sean estos acuerdos los que minimicen las consecuencias de la situación que se ha presentado haremos

subsanación de los defectos que se detecten velaremos por que exista buena fe de las negociaciones aplicaremos el estudio de legalidad a los convenios que les afecten impugnaremos los acuerdos adoptados en el periodo de consulta si se llega a estimar que se han alcanzado mediante fraude dolo coacción abuso de derecho a efectos de su posible declaración

y realizaremos a petición de cualquiera de las partes o por iniciativa propia actuaciones de asistencia nuestro objetivo es la búsqueda de soluciones a los problemas la inspección de trabajo va a cumplir con su cometido en todos y cada uno de los aspectos

los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y trabajadoras del grupo tubos reunidos y que sea desde luego el acuerdo el que impere en todo esto eskerrik asko eskerrik asko

por el éxito de las movilizaciones del ocho de marzo en todos los países en general y en euskadi en particular la huelga laboral ha de ser convocada para ser legal por los legítimos representantes de los trabajadores y trabajadoras sindicatos secciones sindicales delegados de personal comités de empresas o por el propio personal trabajador

los principales sindicatos presentaron diferentes convocatorias o huelgas de veinticuatro de cuatro y de dos horas

la organización del trabajo en aquellas empresas y entidades dedicadas a la prestación de servicios que se consideran esenciales

su elección entre las distintas modalidades la orden de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho firmada por mí garantizaba el mantenimiento de los servicios esenciales durante la huelga general convocada el pasado ocho de marzo y fue publicada en el boletín del seis de marzo

reconoce el derecho a la huelga de los y las trabajadoras para la defensa de sus intereses como uno de los derechos fundamentales

que los derechos más relevantes como la vida integridad física y salud entre otros por lo tanto para evitar

resulta imprescindible dictar las medidas oportunas encaminadas a asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad

ninguno de los derechos fundamentales en conflicto los sectores esenciales en los que establecimos servicios mínimos fueron el sanitario emergencias seguridad educativo transporte

en ningún caso y esto lo quiero resaltar han sido cuestionados por ninguna organización la esencialidad de estos servicios

anterior es evidente que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de los derechos fundamentales ha de venir determinada por una estricta observancia del principio de proporcionalidad y esto también creo que se ajustaba la orden referida

que se vaya construyendo con sentencias que van creando jurisprudencia

convocantes no por todas y cuestionando exclusivamente los siguientes servicios

emergencias y seguridad vial los servicios sociales residencias destinadas a personas mayores el traslado de los usuarios de centros de día tele asistencia residencias de menores no acompañados y centros de intervención social y en el sector

en las medidas cautelares que se plantearon el tribunal estimó parcialmente las pretensiones de la demanda

en el sector de las residencias de la tercera edad cuantificándolas en el cincuenta por ciento de los mismos eskerrik asko

de huelga es la defensa del derecho mismo de huelga

que usted y el resto de parlamentarios y parlamentarias entiendan que en todo momento

tuve la ocasión de acudir a la manifestación de bilbao y la gente que me rodeaba comentaba las dificultades que había tenido para llegar en transporte público hasta el sagrado corazón

aumentado los servicios mínimos del metro en esas horas pues que se hubieran recurrido eskerrik asko